sí evidentemente yo he tenido responsabilidades en el gobierno en función pública

y yo no soy frágil de memoria señora garrido lo he dicho además en mi primera intervención el esfuerzo que ya han realizado los trabajadores públicos de este país igual que los trabajadores de otros sectores económicos muchos y muy duros pero lo que está claro es que

visto euskadi en su contexto el cumplimiento de los objetivos de la estabilidad que por parte de la comunidad autónoma se estaban dando no era necesario aplicar

además de la complejidad que es un tema complejo no es un tema sencillo eso es verdad y que en euskadi la jornada laboral es diferente a la jornada de la age de la administración

aquí lo que hay en realidad y lo he dicho en mi primera intervención y lo reitero es utilizando la excusa el paraguas del real decreto de rajoy aprovechamos el viaje para hacer ajustes económicos objetivo

no necesariamente sobre la espalda de los trabajadores y sobre todo en esta cuestión que estamos hablando de una cuantía que no llega a los once millónes de euros puede ser alcanzado también por la vía de la gestión

u otros departamentos del gobierno pero desde luego estamos observando un retroceso claro en la función pública y en los diferentes sectores de la administración yo acabo de tener conocimiento de una noticia que me preocupa muchísimo y que creo que el resto de miembros de esta cámara también debiera preocuparle alcanzamos un acuerdo histórico en el sector de la justicia en la legislatura pasada conseguimos que la reivindicación histórica de los funcionarios de justicia de ser homologados a los funcionarios

de ser considerados parte de la administración vasca es decir funcionarios vascos no funcionarios españoles como les decían en los gobiernos

el otro día el director de justicia que se sentó en la mesa sectorial con los sindicatos les dijo que ustedes son administración del estado y como son administración del estado no solo no le vamos a aplicar el incremento de jornada anual que hemos aplicado al resto de sectores de la administración vasca sino que ustedes van a tener

en estado puro volvemos a la judicatura española la administración de justicia española y todo español y la pregunta que me hago es que ya lo hará portavoz la portavoz de justicia de mi grupo mi compañera miren gallastegui

el acuerdo de homologación de justicia pero volviendo al tema de la competitividad hay que decir señora garrido que la competitividad no viene solo por el incremento de la jornada laboral

que dice que el gobierno de mariano rajoy está tomando las medidas adecuadas y que van por el buen camino bueno pues en puertas de un nuevo consejo de ministros donde no sabemos a qué recortes vamos a asistir mañana

y en euskadi con la cifra de ciento sesenta y cuatro mil setecientos personas

recortes ajustes hasta el fondo monetario internacional organismos internacionales les están señalando claramente que no es el camino por el cual se va a entrar en la senda de la recuperación rajoy y su ministro de economía dicen a los españoles que a finales de este año vamos a ver la luz al final del túnel y sin embargo

desmintiendo eso o sea ustedes engañan claramente a la población y siguen aplicando esas recetas equivocadas y usted me dice ay señora mendia es que usted cuando estaba en el gobierno y viene el gobierno de zapatero usted aplica la legislación española y cuando es el gobierno de mariano rajoy no

aplicamos el decreto del gobierno de españa en el año dos mil diez porque estaba bien hecho y se ceñía al ámbito competencial del estado que es el salario base

efectivamente han metido la pata y por lo tanto han invadido competencias y por eso es por lo que no aplicamos y fuimos al constitucional desde luego

no de menos salario porque siempre habrá otro país en el mundo que tenga los salarios más bajos que meta más horas que sus condiciones laborales sean pésimas siempre vamos a encontrar en el que producir más barato y con más horas por lo tanto lo que tenemos que hacer en euskadi y en españa también pero a mí me preocupa euskadi estamos en el parlamento vasco es

valor añadido y para eso es la innovación el desarrollo la investigación y la internacionalización y es justo el camino que su gobierno y que este gobierno vasco

las medidas para maximizar la reducción del gasto público en personal

zer dela eta onartu zen de manera unilateral la carta de derecho sociales unilateralmente

se rompió la carta también cuando vosotros dejasteis en suspenso

aipatu duzu que los ahorros económicos

se cuantifican en once millónes de euros el psoe pretendía ahorrar cien millónes de euros en personal cómo se justifica eso

del cinco por ciento que por cierto yo también la viví en primera persona qué ocurre con eso no se adoptó de forma unilateral por zapatero en el gobierno de madrid

en aplicarlo en euskadi entendemos

así es pero también se hacía lo mismo cuando se aplicaba

nosotros desde luego nos acordamos de todos y especialmente de los que lo están pasando peor

de todos desde luego no somos sectarios a la hora de hacer ciertos discursos

al señor maneiro le diría que cada vez usted se está escorando más en la izquierda dentro de poco se va a llegar a tocar casi hasta con bildu

no le gustan las recetas del partido popular pues no sé si le gustarán más las recetas de zapatero

por esa razón al partido socialista desde luego el partido socialista en euskadi se pone la chaqueta autonomista cuando está en la oposición y la chaqueta centralista cuando está en el gobierno y tiene responsabilidad

acataron sin rechistar la rebaja del cinco por ciento y eso sí que era una rebaja y la acataron sin rechistar dónde estaban entonces defendiendo la autonomía y el autogobierno

dónde estaban cuando se retrasó la transferencia de las políticas activas de empleo en una negociación presupuestaria entre urkullu y zapatero que eso si que era una herramienta fundamental

socialista de euskadi a tragar cuando me habla la señora mendia de competitividad le diría varias cosas para ser competitivo

ese déficit público que ustedes dejaron absolutamente

más alto de lo que decían sanear el sector financiero

absolutamente saneado y ahí está la hemeroteca

la seguridad social y desde luego no congelar las pensiones porque aquí si hay alguien que ha congelado las pensiones ha sido el gobierno del partido socialista desde luego lo que es necesario para la competitividad es no gastar lo que no se tiene

qué es necesario para la competitividad la flexibilización de la economía española ese es el camino la racionalización de la administración pública la reforma del sector energético esas son las recetas y la ue la unión europea

que ese es el camino y lo vuelvo a repetir cuando a uno lo eligen para gobernar

es ejercer la responsabilidad y desde luego no mirar para otro lado o hacer dejación de su responsabilidad que es lo que ustedes hicieron

que ahora se están tomando no todas porque si hubieran tomado si quiera alguna desde luego no estaríamos en la situación

que se encontró el partido popular y mire se están poniendo las bases para crecer en un futuro

por eso precisamente por que se están poniendo las bases aunque obviamente queda mucho por hacer queda mucho por hacer y habrá que seguir tomando decisiones y decisiones duras y decisiones que a este gobierno no le gustan pero que sabe que las tiene que tomar

como otros países la prima de riesgo ha bajado y aunque desgraciadamente el nivel de empleo sigue sufriendo el ritmo de destrucción de empleo

no le alegran en absoluto eskerrik asko garrido andrea eztabaida amaituta

entzun nizkion adierazpenak entzun eta gero la dación en pago general

gracias señora presidenta buenos días señorías yo creo que toda la cámara comparte la oportunidad de este

pero yo creo que también es conveniente saber de qué estamos hablando desde una

entiendo que ya saben el sistema de ejecución hipotecaria es un sistema sumarísimo cuando una persona no puede pagar

a esa ejecución y el deudor solamente puede oponerse por dos motivos fundamentales o bien el pago o error en la determinación de la cantidad exigible cualquier otra cuestión que el deudor quiera alegar como nulidad del título cláusulas abusivas etcétera no se pueden ventilar

a un procedimiento declarativo en este caso la de jurisdicción mercantil sin que la tramitación de ese procedimiento mercantil produzca la suspensión de la ejecución

cuando se dicta la sentencia de ese procedimiento declarativo y se le da la razón al deudor ya ha sido su casa subastada

qué es lo que ha ocurrido para que estemos hablando hoy de esto pues que un abogado de barcelona tuvo una idea brillante tuvo la brillante idea de interponer una demanda alegando que los intereses de demora

abonando su cliente ejecutado en un procedimiento hipotecario eran abusivos

esto motivó que el juez concretamente es el juez del mercantil número tres

manifestara sus dudas en cuanto a la conformidad del derecho español con el marco jurídico establecido por la directiva europea

sobre cláusulas abusivas y planteara ante el tribunal de justicia de la unión europea una cuestión prejudicial en la que pedía que se le aclararan fundamentalmente dos cuestiones

limita claramente los derechos de los consumidores y usuarios porque esos exiguos motivos de oposición a la ejecución obstaculizan de manera casi

o recursos judiciales que garanticen una tutela efectiva de sus derechos y por otro solicitaba que el tribunal diera contenido al concepto de desproporción que determinar a qué concepto puede entenderse cláusula abusiva en relación con el vencimiento anticipado los intereses de demora y también la determinación de la liquidación de la deuda por parte del propio y como ya saben el catorce de marzo la sala primera del tribunal de justicia de la unión europea ha dictado una sentencia por la que declara que el derecho procesal hipotecario español vulnera el ejercicio de los derechos de los consumidores y es contrario a lo establecido en la directiva

cláusulas abusivas de los contratos lo que en puridad y en definitiva permite a los jueces españoles suspender esas ejecuciones hasta la resolución declarativa que corresponda

del problema de los deudores hipotecarios pero fundamentalmente el problema es el problema del deudor sobrevenido el deudor que ha podido siempre pagar sus deudas y que por causas de lo que hablaremos después que es precisamente esta crisis que nos está comiendo todo

a la que no puede hacer frente como certeramente dice

no garantice los derechos de quienes afectados por un proceso de ejecución hipotecaria

que cotidianamente en otros juzgados y tribunales se están declarando nulas cuando los procedimientos no son de carácter hipotecario

pero lo material la cuestión principal que es el objeto en sí del debate

subyace a esta proposición es cómo dar respuesta a estas situaciones de endeudamiento sobrevenido cómo capear esta crisis que lo está arrasando

personales familiares que esta crisis interminable está produciendo cómo solucionar esas situaciones de desamparo de miles de familias en este país cómo conseguir que nadie en definitiva en este país se quede sin su vivienda esta sentencia

es la panacea no es la solución para el deudor hipotecario de buena fe no

tiene una trascendencia importante para muchas familias que están inmersas en esta serie de procedimientos pero lo cierto es que no afecta a todas las ejecuciones hipotecarias no define qué es cláusula abusiva y qué no no tiene carácter retroactivo no habla de dación en pago no garantiza en definitiva

es que el legislador estatal mejorase la ley elaborase una ley decente que regule de manera justa equilibrada y repito decente el tráfico de muchas situaciones de nuestras vidas

y que nos permitiera tener expectativas de justicia y de igualdad en la protección de nuestros derechos

era lo que tocaba era lo que toda la sociedad española toda la sociedad vasca todo el mundo mundial está con un grado de movilización desconocido hasta la fecha está pidiendo al gobierno de españa y este de nuevo ha frustrado todas y cada una de las expectativas que tenía cada una de estas personas

corta que es absolutamente insuficiente para abordar en su integridad la situación de los deudores hipotecarios y el desequilibrio de su posición en relación con la posición del acreedor es así de sencillo en definitiva señorías muy

que esas medidas que no le parecen suficientes a la señora

de la cámara pueden hacer más por todos los afectados señorías que esta ley que presumiblemente se aprobará dentro de dos meses después de su tramite por el senado

en definitiva tendremos que seguir dependiendo de la sensibilidad social de algunos jueces o de las ideas innovadoras o brillantes de algunos abogados

coto a esta injusticia para que se cumplan en definitiva todos y cada uno de los puntos que le instamos con esta enmienda transaccional al gobierno de españa al resto de instituciones y entidades directamente interpeladas la enmienda recoge señora beitialarrangoitia absolutamente todos y cada uno de los puntos menos uno que es concretamente

a que el tribunal de justicia de la unión europea estudia los casos de desahucios que han sucedido en aplicación de los artículos que vulneran los derechos

las cosas cuando se piden hay que hacerlas bien es decir la vía para pedir indemnizaciones está en el derecho español es decir usted tiene que conocer

entre personas que celebran este tipo de obligaciones contractuales

en este caso comunitaria es decir de lo que se trata es de hacer viables las peticiones y que en definitiva solucionen

en definitiva señorías yo me quedo con el valor del acuerdo
de ante mano el voto favorable de los grupos eskerrik asko gallastegui anderea

gracias señora presidenta buenos días de nuevo a todos bien como se ha dicho aquí nos encontramos en la peor coyuntura económica a la que hemos tenido que hacer frente desde el inicio

y esa profunda crisis económica como también se ha dicho aquí está arrastrando socialmente a muchas familias a una situación insostenible la principal consecuencia de esta situación es la pérdida de puestos de trabajo lo que provoca falta de ingresos conlleva una espiral personal y familiar que supone la puerta de entrada a la exclusión social y esta critica situación económica está teniendo

pero que se ha disparado de forma exponencial en los últimos cuatro años la pérdida

y yo ya he dicho aquí en otras ocasiones que cualquier persona dotada de sensibilidad y empatía debe ser capaz de comprender lo que esté drama supone y el partido popular lo es así consciente de la gravedad de la situación social provocada

y sensibilizado por la situación social creada en noviembre del año pasado se aprobaba otro real decreto y además se ha tramitado conjuntamente

unido a la iniciativa legislativa popular presentada por la plataforma de afectados por la hipoteca y así

el equilibrio la proporcionalidad y sobre todo el posibilismo porque de lo que se trata es de dar protección sí hipotecario de buen fe sobre todo a los de especial vulnerabilidad

por ciento de las personas que están pagando su hipoteca no se vean afectadas por estas medidas antidesahucio porque hay que legislar para el cien por ciento de los ciudadanos además es necesario no tomar medidas que dificulten en un futuro que los ciudadanos que quieran acceder a una crédito para poder

con unas condiciones inasumibles hay que proteger

del sistema pero es verdad que para muchos esto no es suficiente y que en vez de arrimar el hombro y ayudar a encontrar una solución factible sin que esto conlleve un problema aun mayor se dedican a desgastar al gobierno instrumentalizando la angustia que viven muchas familias

claro que hay que actuar claro que hay que actuar y por primera vez un gobierno ha legislado en esta materia tratando de ofrecer una solución a las situaciones más vulnerables

desprotección pero paradójicamente en este país se vilipendia a quien pretende legislar tratando de ofrecer soluciones a los afectados por el drama de los desahucios

quien más arremete es precisamente el máximo responsable de la situación actual el proyecto de medidas urgentes para deudores hipotecarios hay que resaltar que es un texto que tiene como premisa principal tratar de abrir vías alternativas

o en última instancia si se tuviera que hacer moderar la carga de la deuda que asumieron inicialmente se trata de un proyecto que afronta el problema de una normativa que persigue

las posiciones entre deudores y entidades financieras protegiendo a las personas en situación como decía de especial vulnerabilidad y esta medida va a afectar a familias con ingresos inferiores

al menos dos hijos unidades familiares con menores de tres años a su cargo personas con discapacidad o víctimas de violencia de genero

permitiendo su permanencia en la vivienda se reducen también los intereses de demora

el proceso de ejecución hipotecaria o se incrementa hasta el setenta por ciento el porcentaje de deuda que se cancela con la adjudicación de la vivienda y además para dar solución a estos colectivos el gobierno ha creado un fondo social de seis mil vivienda en régimen de alquiler

sea la última alternativa la última porque la dación en pago supone como décimos la pérdida de la vivienda y van a ser

a ver beneficiadas con este nuevo texto legal

de un gobierno que ha diferencia del anterior se ha mostrado sensible con uno de los principales dramas que nos ha tocado vivir y yo con relación a la iniciativa sí quería decirle a eh bildu que puede quedarse tranquilo la iniciativa de que se adaptasen los requerimientos del tribunal de justicia de la unión europea ya se había hecho

todas estas precisiones y además se ha abierto un plazo de enmiendas una semana más

se hiciese y es más cuando se presentó la iniciativa ya eso se sabía luego yo creo que desde luego ha hablado de vergüenza pero yo creo que lo que es vergonzoso es el cinismo político de eh bildu que no tiene limites exige

cuando su actual grupo y sus antecesores políticos han dado incontables muestras de su desprecio hacia los tribunales de justicia no vamos a admitir la más mínima lección de ética

un instrumento principal de actuación política porque el gobierno de españa como les decía va a acatar la sentencia

pero es más muchos de los elementos de la misma ya estaban incluidos de ley y volviendo al inicio de mi intervención es evidente que esta situación no surge de forma espontánea sino que por el contrario tiene unos antecedentes que todos conocemos no se trata de entablar una agria discusión en torno y tú más

lo que no vamos es a permanecer callados mientras quienes originaron el problema y no hicieron absolutamente nada

hay que recordar que durante la época del gobierno socialista crecieron los desahucios un doscientos por ciento y que según los datos del banco de españa solo el uno por ciento de los procesos de desahucio se han iniciado en el dos mil doce

ético en absoluto instrumentalizar la angustia de miles de familias por parte de quienes tienen un alto grado de responsabilidad

promovidas por parte de quienes mantuvieron una posición absolutamente omisiva en torno a este asunto y como la memoria es frágil

pero el diario de sesiones del congreso de los diputados no y ese no se puede borrar

algunas frases ruego una vez más que repiensen su postura y no creemos falsas expectativas a los ciudadanos con políticas de fiestas cada vez que hablamos

estamos creando expectativas en unas personas que están vivienda una situación muy difícil

sabemos que jurídicamente la dación en pago con efecto retroactivo es imposible

encarecería las hipotecas y no vamos a poner en marcha ni vamos a apoyar ninguna iniciativa

busquemos entre todos fórmulas reales pero hagámoslo manteniendo la seguridad jurídica y no haciendo que los precios de la vivienda suban que suban las hipotecas

a las familias trabajemos de forma seria y rigurosa los prestamos ahora impagados se suscribieron en unas condiciones y en un marco jurídico que ahora no puede verse alterado

daría lugar a un problema aún mayor la medida propuesta agravaría la situación económica en la que nos encontramos por cuanto las entidades financieras

por tanto más desventajas que soluciones pocas y riesgos excesivos

inoportuna y poco o nada eficaz genera falsas expectativas que lanzaría un mensaje a los mercados

y que generaría mayores problemas de los que solucionaría les pido que se sumen aunque sea por una sola vez a ese ejercicio de responsabilidad bien

no proceden de ningún responsable del grupo popular todas y cada una de estas frases

del partido socialista y ahora se está hablando de modificar la legislación procesal de los desahucios sabe qué hicieron ustedes señores

vamos a agilizar los desahucios esa fue la frase de la señora chacón cuando era ministra de vivienda lo que hicieron es aprobar una ley de desahucios exprés y crearon diez juzgados especializados para agilizar procesos desde luego yo termino poniendo en valor la actuación del gobierno del partido popular

que están vivienda muchas personas lo que está haciendo es actuar

legislar y no permanecer impasible desde luego

como le decía la señora garrido hay que aplicar determinadas recetas no desde luego las que ustedes aplicaron esa receta es hablar menos

muchas gracias presidenta lo cierto es que tres meses después volvemos a hablar en esta cámara

a la ley hipotecaria española obviamente compartimos con otros grupos

a la legislación española esa sentencia recientemente emitida por el tribunal de justicia de la unión europea sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores tal como expresa nuestra enmienda y como recoge la enmienda de totalidad

una mayoría de grupos en concreto una enmienda transaccional que hemos firmado con el grupo nacionalistas vascos con el grupo socialistas y con el grupo popular yo creo que lo que este gobierno de españa debería hacer señora llanos y restantes miembros parlamentarios además de lo

desde europa yo creo que este gobierno de españa lo que debería hacer es observar y escuchar las exigencias de los ciudadanos

lo que no hace porque el actual gobierno de españa apunte bien señora llanos está ciego y sordo en relación a las necesidades reales

y sordo en relación con el problema de los desahucios en españa

ya en dos mil ocho presentamos y registramos desde upyd una iniciativa en el congreso de los diputados para limitar los intereses de demora en los prestamos hipotecarios

por todos los grupos de la cámara pero que el gobierno de españa del año dos mil ocho no tuvo en cuenta y no llevó a efecto en fin

en este punto el partido popular y el partido socialista se parecen mucho se han parecido mucho ambos durante estos últimos años porque ni uno

para salvaguardar los intereses de los ciudadanos y desde luego para resolver el asunto de los desahucios efectivamente se han parecido mucho ambos partidos políticos ambos gobiernos han estado ciegos y sordos y han dado la espalda permanentemente a los ciudadanos

recientemente hemos podido observar qué es lo que ha ocurrido en el congreso de los diputados en relación a la ilp y al debate relacionado con la ley sobre desahucios aprobada

del partido popular es decir nosotros podemos instar al gobierno de españa tantas veces como sea necesario a llevar a cabo las reformas legales que se nos ocurran

a una hipoteca que en su momento pudieron suscribir pero el problema insisto es que este gobierno está ciego sordo y no escucha absolutamente a nadie no escucha ni a los ciudadanos ni a los grupos de la oposición

propuestas razonadas razonables y sensatas para resolver este problema el partido popular ha dicho que no a todas esas iniciativas no

no escucha a los grupos de la oposición y se niega a resolver el problema de los desahucios dando muestras de una obcecación irracional lo cierto es que enseguida salen a defender al sistema financiero pero dan la espalda permanentemente a los intereses de los ciudadanos dando muestras de una insensibilidad absolutamente insultante y bochornosa

en españa es el siguiente se trata de resolver la situación de injusticia en la que se encuentran personas atrapadas en una crisis que ellos mismos no crearon

que en su momento sí pudieron suscribir este es el problema que hay que resolver en españa y el problema es relativamente sencillo el problema es que sorprendentemente el partido popular con su mayoría absoluta en el congreso de los diputados

cualquier tipo de medida que vaya en esa dirección a pesar de que diferentes grupos permanentemente le han venido planteando diferentes opciones para resolver este problema pero no escucha ya digo que la solución es relativamente sencilla el problema es que este gobierno no

no escucha a los ciudadanos no escucha a los diferentes grupos que recientemente han podido presentar diferentes propuestas casi todas ellas muy interesantes

de hecho se produjo durante ese proceso un progresivo acercamiento entre la mayoría de los grupos de la oposición que llegaron finalmente a coincidir en cuáles eran las modificaciones legales no demasiado complicadas y las medidas que serían indispensables aprobar pero el gobierno de españa se niega permanentemente a tomar en cuenta esas recomendaciones a impulsar esas medidas haciendo gala insisto de una insensibilidad

para nosotros el problema de resolver la situación de injusticia en la que se encuentran miles de ciudadanos que no pueden hacer frente a hipotecas que en su momento sí pudieron suscribir

poner en marcha la legislación o una legislación de segunda oportunidad es decir

un mecanismo jurídico para lograr que los particulares puedan parar el lanzamiento hipotecario

o negociando la hipoteca o renegociando el crédito pendiente con la entidad bancaria es decir se trata de dar una oportunidad a esos ciudadanos que no pueden hacer frente a sus deudas de rehacer su vida económica

de una vivienda ese es el objetivo fundamental el partido socialista ya sabemos que no lo hizo vamos a pensar en el presente y en el futuro el problema es que el gobierno actual que podría hacerlo sin excesivas dificultades tampoco hacerlo y vive enrocado en sus planteamientos y sigue dando la espalda al conjunto de los ciudadanos se niega a resolver un problema relativamente sencillo de resolver si se quisiera pero este gobierno no quiere en fin esto es lo que nosotros hemos planteado en nuestra enmienda de totalidad

esa enmienda de transacción que es una enmienda de mínimos que no se recoge ni de lejos todo lo que el gobierno debería hacer resolver el problema de los desahucios en todo caso en esta cámara en el congreso de los diputados seguiremos insistiendo el gobierno de españa está ciego y sordo no va a escuchar a nadie absolutamente

no escucha absolutamente a nadie vive de espaldas a la sociedad no atiende no quiere resolver los problemas de los ciudadanos pero nosotros desde aquí y desde el congreso de los diputados seguiremos insistiendo para ver si ustedes se dan cuenta que se pueden impulsar determinadas modificaciones legales para resolver este problema

se puede hacer y nosotros lo seguiremos intentando haber si conseguimos convencer a esa mayoría absoluta de diputados del partido popular

desde el congreso de los diputados nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria

es por ello por lo que planteamos una modificación de la normativa vigente desde un planteamiento integral que aborde todas las

se aborda la posibilidad de oposición en el procedimiento judicial para que los jueces puedan actuar en los casos de cláusulas abusivas en los contratos o anti irregularidades en el procedimiento de desahucio eta konkretuki

la directiva noventa y tres barra trece

de los contratos celebrados con consumidores debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un estado miembro que al mismo tiempo que no provee en el marco de procedimiento de ejecución hipotecaria

basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del titulo ejecutivo no permite que el juez que conozca el proceso declarativo competente

entre ellas en particular la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria cuando acordar tales medidas sea necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final beste aipamenik ere egiten du ordea

nos recuerda como el sistema de protección que establece la directiva se basa en la idea de que el consumidor se haya en situación de inferioridad

en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información

dispone que las cláusulas abusivas no vinculan al consumidor como la sentencia indica

el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes

que pueda reestablecer la igualdad entre estas otro de los aspectos que recuerda es como el tribunal de justicia ha subrayado en varias ocasiones que el juez nacional deberá apreciar de oficio

cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la directiva y de este modo subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional

tan pronto como disponga de los elementos de hecho y derecho necesarios para ello si bien el objeto de recurso se dirige sobre el proceso declarativo vinculado al procedimiento de ejecución hipotecaria y por lo tanto la sentencia se ciñe a ello ez da komeni nire iritziz

según indica la sentencia el artículo tres apartado uno el concepto de desequilibrio importante en detrimento del consumidor debe apreciarse mediante un análisis de las normas nacionales aplicables a la falta de acuerdo entre las partes para determinar si y en su caso en qué medida el contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable que la prevista

así mismo resulta pertinente a estos efectos llevar a cabo un examen de la situación jurídica en la que se encuentra dicho consumidor en función de los medios de que dispone con arreglo a la normativa nacional para que cese el uso de cláusulas abusivas para determinar si una cláusula si se causa

debe comprobarse si el profesional tratando de manera leal y equitativa con el consumidor

que este aceptaría la cláusula en cuestión en el marco de la negociación individual honegatik gure proposamenean legediaren ahalik eta

respeto a los consumidores arlo honetan

gracias señora presidenta

señorías que me quedaba con el acuerdo y

llanos la verdad es que en el ámbito personal en el ámbito de la dialéctica interpersonal

por lo tanto no voy a entrar al trapo de contestarle a usted estas cosas sin prejuicio de que pudiéramos hablar por ejemplo de la capacidad legislativa de algunos de sus ministros léase por ejemplo

en orden a modificar a la baja la categoría de los derechos de los ciudadanos pero voy a ceñirme al asunto que se debate

seguramente llegamos tarde y por tanto seguramente tendremos que reconocer varios errores del pasado en orden a esto pero hay que darle a dios lo que es de dios y al cesar lo que es del cesar

y que ya iniciamos un camino en el trabajo para conseguir la mejora de las condiciones de todos los deudores hipotecarios tengo que recordarles por ejemplo como usted sabrá

actas del congreso de los diputados que nosotros presentamos una proposición de ley en octubre en la cual solicitábamos una serie de medidas

muy bien desarrollada que retiramos para que se tramitara la iniciativa legislativa popular cuya

endeudamiento y la insolvencia también le voy a recordar

que una de las primeras iniciativas que se tomaron por parte del grupo socialista en el gobierno en el año dos mil once a finales del gobierno

fue subir hasta los mil euros la cantidad inembargable

hay que hacer las manifestaciones en fin con un poquito de cuidado y un poquito de respeto porque no se puede permitir manifestaciones torticeras los planteamientos que

exactamente correspondientes a los procedimientos de desahucio por falta de pago de las rentas

por favor churras con merinas en cualquier caso lo cierto es que ustedes

tomaron para empezar a mover esto no admitieron esta preposición de ley que nosotros planteábamos

redactaron este decreto seis barra dos mil doce de nueve de marzo que definía

para poder acogerse a las medidas previstas en el código de buenas prácticas esto es así se lo está diciendo todos los grupos

de la cámara lo que hace además que ese colectivo que pueda resultar beneficiado sea muy reducido casi testimonial y que la mayor parte de los afectados con escasos recursos no puedan beneficiarse de las medidas que se recogían en ese decreto pero en vez de enmendalla fastidialla

de recapacitar y intentar mejorar la situación lo que hacen es un nuevo real decreto del que causa

exclusivamente por ustedes y en sede de comisión de economía

lo que tampoco resuelve la situación fundamentalmente por tres razones primero porque el establecimiento de nuevo de un ámbito subjetivo muy restrictivo que exige además de la concurrencia de una determinada situación económica

vulnerabilidad descritas estas con criterios muy estrictos a lo que se une la exclusión de otras situaciones que hubieran exigido la misma protección no soluciona el problema la segunda porque el objetivo principal es muy limitado pues solo afecta la paralización del lanzamiento es decir la paralización del desahucio

cuando la vivienda ya ha sido adjudicada y por tanto el deudor ha perdido su propiedad y la tercera el decreto ley solo retrasa en el tiempo incluso ahora va como consecuencia la no paralización de intereses el problema que pretende solucionar ustedes le han dado a esta ley un nombre muy bonito muy interesante precioso la ley de medidas de protección a los deudores reestructuración de la deuda y alquiler social

ni permiten la reestructuración de la deuda y tampoco se prevén medidas de alquiler social que puedan solucionar el problema de estas familias yo me quedo de nuevo con
el acuerdo y solicito de nuevo el apoyo de todos los grupos de la cámara gracias eskerrik asko

gracias de nuevo señora presidenta vayamos por partes

lo del ciego y sordo lo utiliza absolutamente en todos los puntos

un único parlamentario y que improvisar debates o tener debates distintos pues le es complicado y utiliza el mismo lenguaje

esa actitud de absoluto populismo de quien siempre ha estado en la oposición lo que me extraña es de una persona como la señora díez que también estuvo en el gobierno claro que en esos casos

y parece que upyd está abocada siempre

esas conductas de exhibicionismo político a las que nos tiene acostumbradas en esta cámara

es que esperemos que se mantengan en la oposición porque si llevan sus recetas populistas al gobierno desde luego nos iría bastante mal

han admitido pudiendo no haber admitido ninguna enmienda verdad porque

ha admitido cincuenta enmiendas cincuenta enmiendas de todos los grupos del grupo socialista de convergencia y unió de izquierda plural de upyd

para estar ciego y sordo y no escuchar a nadie la verdad es que choca un poco y hablaba la señora

nos llevamos bien pero me decía que no iba a entrar en el y tú más y que no

leído es que no tiene nada que decir se las he sacado de la

del congreso de los diputados que algunas pueden ser ciertas

en que nosotros en su momento había determinados puntos de esos que estábamos de acuerdo con ustedes y ustedes han pasado del gobierno a la pancarta

y están al igual que el señor maneiro instrumentalizando el sufrimiento de muchas familias porque mire usted dice que beneficios pocos mire la diferencia está en que las medidas

el gobierno de andalucía con las medidas que ha puesto en vigor esas que ha vendido a bombo y platillo doscientos personas

vacías y esas si que pueden dar solución a los desahucios pero no solo había frases es que ustedes han votado en contra de un montón de resoluciones

en el dos mil diez varias veces en el dos mil once también varias veces en contra de lo que ahora como les decía en esa postura de pasar del gobierno a la pancarta enarbolan

yo es que no le voy a explicar por que ya se lo he dicho parte de lo que pedimos está muy bien y nosotros como también hay peticiones al gobierno vasco a las entidades financieras y nos hemos sumado al acuerdo fundamentalmente porque parte de lo que se pide en esa enmienda es que ya está hecho que ya está incorporado al proyecto de ley con lo cual por pedir y por acordar en un tema sobre todo este tan sensible desde luego pero que ya le digo que está hecho y que parte de esas enmiendas que yo supongo

la iniciativa legislativa popular también el resto de los grupos al presentar sus enmiendas pues ya le he dicho cincuenta enmiendas con lo cual tener en cuenta tener presenta la iniciativa legislativa popular la hemos tenido y dejo para el final

hablan del cumplimiento de la sentencia y a hablado después

del tema de la dación en pago ustedes

les gusta fomentar el incumplimiento de las leyes no sé si lo que quieren fomentar es la cultura del impago

pero ustedes en eso tienen bastante poca experiencia porque gobiernan para algunos pero además

foral de gipuzkoa y el ayuntamiento de donosti trabajarán con entidades financieras para el pago de obligaciones cobro de recibos me imagino que como esas entidades financieras también ejecutarán desahucios

y romperán todo tipo de relación con las entidades financieras y ustedes decían que les gustaría ver un papel a nosotros también pero el papel que nos gustaría ver puesto

sobre blanco es que ustedes de una vez condenan a eta nada más muchas gracias eskerrik asko

sí gracias yo la verdad no sé si poner en valor el acuerdo o más bien lamentarme

de mínimos tan de mínimos que incluso la ha firmado el partido popular es decir hemos firmado una transaccional

que la ha firmado el partido popular lo cual resume bastante bien que efectivamente será una transaccional claramente insuficiente para resolver el tema de los desahucios lo hemos visto durante los últimos meses en el congreso de los diputados lo acabamos de ver la semana pasada en el congreso de diputados qué tipo de ley

el partido popular únicamente con sus votos y lo cierto y lo que yo quería decir e insisto es que el partido popular no modifica las leyes necesarias

es una transaccional claramente insuficiente en fin está muy bien esto de plantear

y que se tenga en cuenta la sentencia que viene de europa está muy bien pero efectivamente es insuficiente porque se deben

los diferentes grupos están bastante de acuerdo

era lo que nosotros habíamos planteado en esa enmienda de totalidad

que sean necesarias para garantizar una segunda oportunidad para los deudores hipotecarios insolventes sea por la vía de la ley concursal o por la vía de la ley de enjuiciamiento civil o por cualquier otra similar que incentive la renegociación de una hipoteca o la dación en pago

con un resultado semejante creo que esta es la clave dar una nueva oportunidad

y disfrutar de una vivienda efectivamente se asumieron algunas enmiendas de los grupos de la oposición cincuenta dice usted algunas de ellas nuestras pero no se incluyó lo fundamental que debe hacerse y en concreto creo que está perfectamente claro en esa enmienda de totalidad que nosotros habíamos presentado finalmente nosotros propusimos se incluyera en esa enmienda de transacción en fin no se quiso porque el debate se quería centrar en la sentencia europea así ha sido quizás deberíamos haberla mantenido esa enmienda en todo caso

señora llanos creo que la situación es gravísima creo que las medidas legales que pudieran impulsarse no son demasiado complicadas se pueden hacer

es así es cierto es una obviedad pero en todo caso hay que pensar en el día de hoy y en el día de mañana se pueden hacer muchas cosas en fin yo llamo a la sensibilidad

lo que está pidiendo la ciudadanía en la calle y lo que están pidiendo el resto de grupos una sensibilidad que efectivamente no tuvo el partido socialista cuando gobernó

no es cuestión de mirar atrás permanentemente aunque a veces es bueno recordar lo que se hizo y lo que no se hizo en todo caso creo que el gobierno de españa sigue estando

porque no impulsa las reformas legales necesarias para resolver este problema hay un acuerdo es un acuerdo de mínimos es un acuerdo insuficiente seguiremos insistiendo para defender esas medidas que nosotros consideramos necesarias nosotros no hacemos populismo defendemos aquello en lo que creemos aquí y en el congreso de los diputados y lo seguiremos haciendo

eta ez dut uste era oso positiboan denik bestalde también se ha hablado sobre

la propuesta de la segunda oportunidad no es que no se quiera

se ha tratado de buscar un acuerdo en base a las dos sentencias y sobre ese aspecto los acuerdos firmados el veinticuatro de enero se introducían fórmulas por esa vía incluso nuestra postura en el congreso de madrid

guztioi la iniciativa que hoy presenta el grupo socialista y para la que hay una transacción con el grupo

la cual agradezco trata de evitar que se impida el acceso al arte por motivos económicos por dificultades económicas de quien

no es pasar un rato sino que el arte nos interpela

evolucionar como ciudadanos nos enriquece desde el punto de vista democrático y personal y por eso como está sostenido en su mayoría en el caso de los museos por fondos públicos es imprescindible garantizar que nadie quede excluido de ese bien motivos económicos en esto estamos todos de acuerdo en euskadi tenemos una ley de museos que obliga a todos aquellos museos de titularidad autonómica a que abran con carácter de gratuidad un día

así se hace pero la mayoría de los museos no son de carácter autonómico pero sí están sostenidos con fondos públicos por ejemplo el guggenheim el guggenheim

recibe para su sostenimiento año tras año fondos públicos y sin embargo

y no solo de euskadi que no tiene un día a la semana ni siquiera una franja horaria varios días a la semana para permitir el acceso gratis de los ciudadanos algo que es una tendencia internacional por esa consideración como decía de utilizar

como son los bienes culturales es verdad que hace poco ha incorporado la posibilidad de que entren los parados sin abonar la entrada pero con carácter general no es así además está ocurriendo que el número de personas con dificultades para utilizar

y por eso la propuesta recoge a una serie de colectivos como son pensionistas que cobran una pensión muy baja o las personas desempleadas

renta de garantía de ingresos profesores o aquellos universitarios que por razón de formación necesitan acceder incorpora todos esos colectivos esta transacción y además deja abierta la puerta a que la administración

para incorporarlos respondiendo a las necesidades de la época y a la tendencia internacional de facilitar como digo el acceso

servicios para acabar solo quiero decir que no es además un quebranto para las cuentas de los museos

colectivos el acceso gratuito el visitante por gran mayoría

el visitante tipo es alguien que trabaja que tiene entre veinticinco y treinta y cuatro años estudios superiores y además mujer

y ese además dentro de las condiciones que marcamos en la transacción a la que hemos alcanzado no tiene que pagar no va a haber quebranto porque se incorporen otros colectivos que además generan hábito y pueden arrastrar a otras personas a otras personas de todos los visitantes los jubilados por ejemplo

y no todos ellos entrarían gratis porque depende de sus condiciones económicas por lo tanto

si algún museo dijera eso es un derecho ciudadano responde a la utilización de los fondos públicos de la forma más eficaz posible y

para los gobiernos y para todos los ciudadanos algo prioritario en cuanto

sí muchas gracias señora presidenta con su permiso desde el escaño para valorar esta

yo creo que sí que es cierto que entronca con una necesidad que podemos identificar y sobre la que este parlamento se puede posicionar y hacer que tanto el gobierno vasco como el resto de las administraciones públicas

definido también en esta proposición no de ley una enmienda no de totalidad una enmienda de modificación de adicción porque este debate

del parlamento vasco en relación con la gratuidad de determinados colectivos profesores universitarios estudiantes de humanidades de arte de historia

no se ha hecho nada de esa cuestión que aprobó este parlamento esperemos y desde luego vamos a estar vigilantes a que el gobierno sí que actúe en lo que es implantar esta gratuidad a estos colectivos y a los que se han añadido fruto de la
enmienda que hemos presentado y que agradecemos también esa disposición del señor reyes muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

que se debate en este último punto del orden del día hay que mencionar que cuando los integrantes de esta cámara algunos estáis aquí se elaboró la ley siete barra dos mil seis de museos de euskadi seguramente porque la situación socio económica de aquel momento

a aprobación pero es evidente que dicha situación desafortunadamente ha cambiado de manera muy significativa y por eso hoy en día debemos ser sensibles y solidarios

y esto es así en materia general tenemos que demostrar esa sensibilidad y solidaridad social en materias básicas prioritarias los considerados servicios públicos esenciales intentando garantizar así los logros obtenidos en las últimas décadas en la búsqueda del objetivo del mayor grado de bienestar posible para nuestra ciudadanía

que se ha marcado como hoja de ruta el actual gobierno vasco hay otras cuestiones de otra entidad en las cuales también hay que demostrar una sensibilidad y practicar un ejercicio de solidaridad a fin de potenciar el desarrollo personal y en este caso concreto que nos atañe con el ánimo de fomentar el acceso

aún más si cabe en el caso de aquellas personas que tienen o cuenta con menos recursos económicos en definitiva con los que peor lo están pasando en la actualidad y creo

de las visitas para las personas que certifiquen estar en situación legal de desempleo incluso antes de que se debata en este parlamento por lo que cabe felicitar al gobierno vasco y a su consejera

a repetir lo que ya se ha dicho nosotros presentamos una enmienda de la totalidad

de mejorar lo inicialmente planteado en

en materia de titularidad o participación en museos

que los grupos destinatarios pues deben estar en una situación que pudiera ser fácilmente acreditable en aras a que la tramitación sea prácticamente automática

hain zuzen ere por ello y siendo sensibles a esta demanda social y necesidad de acercar

hemos hecho un esfuerzo como decía la representante de bildu en llegar a un acuerdo

los cuatro colectivos planteados por el representante

se ha añadido lo mencionado por el grupo popular en su

febrero del dos mil doce que fue aprobada en comisión de cultura aunque referida al museo guggenheim y también se a abierto el abanico a que

especialmente afectados por la actual situación económica y que no estén recogidos en la propuesta y finalmente

felicitarnos por el acuerdo que creo que es lo importante y agradecer el que hayamos llegado a esta transaccional eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna

sestaotarrek lan aukerak izatea según los informes realizados por diversos operadores jurídicos y que han sido presentados a los servicios de competencia europeos la cuestión está clara no se debe proceder a la recuperación de las ayudas supuestamente otorgadas mediante el anterior sistema de tax lease en la medida en que sería contrario a los principios de confianza legítima

existiendo numerosos antecedentes que lo avalan tras dos años y medio de inactividad y con seis a nuestras espaldas estamos a la espera de la resolución del procedimiento de investigación la industria naval española necesita de manera urgente la terminación de este procedimiento los astilleros y en especial cnn no pueden continuar ni un mes más sin contratar

ningún armador firmará un nuevo contrato ni por supuesto los bancos o cajas facilitarán financiación por tanto si la comisión no toma una decisión de manera inminente

la destrucción masiva de empleos premiazkoa da beraz irtenbide bat eta

tres solicita al gobierno vasco y al gobierno de españa que utilicen todos los medios a su alcance

para que resuelva de manera inmediata el expediente sobre la devolución de las cantidades afectadas por el anterior sistema de tax lease español el parlamento vasco dará traslado de esta declaración institucional

a primar y al comisario de la competencia europea gai zerrenda agortuta